buenas tardes señor lehendakari hemos querido traer este asunto

nos parece un asunto lo suficientemente importante como para que este parlamento pueda posicionarse y lo cierto es que la intención que teníamos nosotros es que fuéramos capaces una mayoría de grupos de acordar un texto lo suficientemente claro y por otro lado contundente

rechace la desanexión del barrio de igeldo del municipio de san sebastián desgraciadamente no ha sido posible porque el partido nacionalista vasco desde un principio

pretendido y ha conseguido quedarse solo en la defensa de su enmienda

es muy probable que en los próximos minutos terminemos firmando una transaccional ya digo que el partido nacionalista vasco

no negociar y no firmar una transaccional que va por otro lado en la línea de lo que el propio partido nacionalista vasco ha defendido tanto en las juntas generales de gipuzkoa

dará las explicaciones oportunas para haberse negado decididamente a firmar esta transaccional alguno viendo la proposición no de ley de upyd en la parte

se pregunte si efectivamente hay tantas razones para oponerse a la desanexión o a la independencia del barrio de igeldo en relación a san sebastián nosotros pensamos que sí

gran número de razones para que una mayoría parlamentaria se hubiera posicionado claramente en contra y están señaladas ahí proponíamos

por ser económicamente ineficiente es decir igeldo sería inviable

los servicios públicos que se prestarían a los ciudadanos de igeldo serían peores que los que reciben en la actualidad y perjudicaría también al conjunto de los ciudadanos donostiarras por ser políticamente inconveniente porque

otros barrios de san sebastián o de otras ciudades vascas sigan por ese camino que a nosotros nos parece claramente contraproducente

porque nos parece socialmente contraproducente genera división y enfrentamiento legalmente irregular es un hecho que contraviene la normativa

antidemocrática no podemos olvidar tampoco que hay una mayoría de grupos políticos tanto en las juntas generales de gipuzkoa

que se oponen claramente a la desanexión a la propia desanexión

esta desanexión lo cierto es que el diecisiete de diciembre de dos mil trece el diputado general de gipuzkoa

la decisión unilateral de la diputación foral de gipuzkoa de desanexionar de san sebastián el barrio de igeldo y su constitución como nuevo municipio

un mes después de haberse celebrado en igeldo la consulta popular no vinculante lo cierto es que garitano para justificar esta decisión

y cita el derecho a decidir por eso consideramos que este asunto es lo suficientemente relevante como para que se debata aquí la diputación foral de gipuzkoa deroga el decreto foral seis barra dos mil diez de dieciséis de marzo que señala que igeldo no cumple las condiciones necesarias para constituirse en municipio

cumple y señala que la firme voluntad de la ciudadanía para ser un pueblo es el mejor indicador de su capacidad para serlo cosa que choca evidentemente con la normativa vigente otra vez por lo tanto defendiendo el derecho a decidir y lo cierto es que bildu lo que ha pretendido hacer con este asunto es

a igeldo utilizar a las gentes de igeldo como banco de pruebas en su defensa del disparatado y absurdo derecho a decidir que defienden los

esta decisión unilateral recibió críticas contundentes de todos los partidos políticos críticas contundentes del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi popular el propio gobierno vasco pidió respeto a la normativa vigente cosa que nos parece un asunto ciertamente interesante la delegación del gobierno pidió la nulidad del decreto foral por su parte el ayuntamiento y las juntas generales se posicionan claramente en contra de esta decisión solo bildu apoya la medida

de los servicios jurídicos del ayuntamiento de san sebastián y existe también un informe de los servicios jurídicos del gobierno foral que emiten un criterio contrario

y el propio secretario municipal del ayuntamiento de san sebastián realiza un informe demoledor en contra de la decisión tomada por el diputado general hay una mayoría democrática que se opone tanto en el ayuntamiento de san sebastián

a esta decisión ya digo que hay infinidad de razones las he ido señalando no podemos olvidar sin ir más lejos que la propia foral de gipuzkoa de demarcaciones territoriales señala que se admite la segregación de parte de un municipio para

la propia normativa foral de álava de demarcaciones territoriales señala un mínimo

y en relación a la norma foral de bizkaia de demarcaciones territoriales no se admite la segregación

uno nuevo solo para unirse a otro existente solo en ese caso es decir

en esto las normas forales distintas en cada territorio señalan que cada municipio que quisiera o cada barrio que quisiera

un nuevo ayuntamiento necesita un número de habitantes mínimo lo que viene por lo tanto a plantear municipios o barrios con menos habitantes efectivamente no serían viables por cierto evidencia también este hecho si observamos las distintas normas forales que en euskadi conviven tres sistemas de organización municipal lo cual ciertamente a nosotros nos parece

corregir lo cierto es que la decisión de bildu fomenta la desigualdad la decisión de bildu al conjunto de los ciudadanos y responde a intereses particulares y partidarios trata de defender y poner encima de la mesa el derecho

vasco igeldo es un banco de pruebas para bildu una especie de experimento bildu utiliza a los ciudadanos a mayor gloria de su proyecto político por eso nosotros considerábamos que es tan importante que este asunto fuera tratado en este parlamento por lo tanto hay razones de todo tipo oponernos a la segregación razones jurídicas razones económicas o de eficiencia razones de prestación de servicios públicos razones democráticas mayorías tanto en el ayuntamiento de san sebastián como en las juntas generales de gipuzkoa que se oponen a esta decisión razones

del derecho a decidir defendido por los nacionalistas y razones formales se realiza vía decreto y sin consenso y lo último que tenemos es la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco que suspende la desanexión de igeldo

firme por lo tanto un cúmulo de razones como para que este parlamento pudiera haberse manifestado o se manifestara mayoritariamente en contra de esta decisión los diferentes grupos políticos me imagino que pondrán encima de la mesa

importantes y todas estas razones ponen encima de la mesa

de igeldo es una medida contraproducente para los ciudadanos y para nosotros esto es lo más importante por lo tanto firmaremos en los próximos minutos con el partido popular y con el partido socialista de euskadi una enmienda de transacción que recoge básicamente estos principios y que dice que no estamos de acuerdo con lo que se ha pretendido hacer con lo que se quiere hacer ni con la forma ni con el fondo el partido nacionalista vasco ha preferido quedarse fuera

no es el responsable de que tengamos que debatir esto hoy

el señor maneiro pero sí es usted responsable de determinadas cosas bueno de todo lo que ha dicho y determinadas afirmaciones claro

pero venir a este pleno para tener que escuchar en relación al barrio de igeldo y su

hipotética desanexión de la ciudad de san sebastián tener que oír bueno después de haber dicho que

pero hablar en relación de igeldo un barrio de la ciudad de san sebastián

hablar del interés económico la fuerza la imposición niega la voluntad de libertad del barrio de igeldo históricamente esto es una cosa

la metrópoli san sebastián como opresora de los pobres ciudadanos

establecer si les parece señorías un poco de sensatez en este debate ya que el señor maneiro nos ha traído hoy aquí

este debate se lamentaba el señor maneiro no entendiendo por qué el partido nacionalista vasco no apoya la enmienda de transacción a la que hemos llegado usted

que incluso varios portavoces del partido nacionalista vasco a lo largo de estos años largos en los cuales bildu gobierna

no han ocultado y es que el partido nacionalista vasco se mueve en un equilibrio incomodo

a decir en algunas ocasiones unas cosas a ser muy contundente cuando toca con determinados gobiernos de bildu y en otras

ni les interesa la foto de la sensatez que es la que representaría apoyando

en ese difícil equilibrio en ese forzado equilibrio al final quienes se ven perjudicados son los ciudadanos en este caso los donostiarras

un cálculo electoral y político un cálculo estratégico político del partido nacionalista vasco en gipuzkoa al que no le importan los perjuicios que genera

en los guipuzcoanos y en los donostiarras y hoy es un claro ejemplo de eso de cómo los cálculos electorales del partido nacionalista vasco de no querer enfrentarse con bildu

provocan problemas a los guipuzcoanos provocan problemas

en el parlamento vasco por lo tanto yo entiendo que usted se sorprenda

pero la realidad es que no nos debe de sorprender qué es lo que sucede en san sebastián

para los que no tienen la inmensa fortuna de ser guipuzcoanos y desconocer en directo lo que nos esta pasando en san sebastián

bildu anuncia su intención de llevar a cabo la desanexión del barrio de igeldo del oprimido barrio de igeldo con respecto a la metrópoli de san sebastián

nueve de noviembre del año dos mil trece convocan una consulta popular

para los vecinos del barrio de igeldo que nos anuncia que no va a ser

vinculante hombre no podía ser vinculante porque han podido votar

porque no hay un censo oficial al que se hayan acogido y porque no se contempla en ninguna legislación alguna conocida en el occidente moderno que una

como se convocó por parte de la diputación foral de gipuzkoa es decir dicho de otra manera es una consulta

democrático ni jurídico sigue el relato desde el ayuntamiento de san sebastián los grupos municipales de la oposición

también el partido socialista y el partido popular rechazan desde el primer momento

que unilateralmente contra el criterio de san sebastián la diputación foral de gipuzkoa lleva adelante y se solicita al secretario municipal esta figuras que ustedes les importan relativamente poco pero bueno es una figura que al final tiene que informar sobre la adecuación jurídica de los actos y de las decisiones que se toman en los ayuntamientos

se solicita al secretario municipal que emita un informe sobre las pretensiones de la diputación y el secretario municipal que además de ser un hombre muy competente es un hombre con formación jurídica

las pretensiones de la diputación foral de gipuzkoa de llevar adelante la segregación unilateral del barrio de igeldo sin el acuerdo sin el respaldo de la ciudad de san sebastián son un despropósito no lo dice él esto es cosecha propia

ilegalidad es decir la diputación foral de gipuzkoa se pasa por el arco del triunfo la voluntad popular de la ciudad de san sebastián expresada en su ayuntamiento

una vez celebrada esta consulta el diputado general de gipuzkoa en un ejercicio de triple salto mortal jurídico

el decreto foral seis barra dos mil diez que entre otras cosas efectivamente entre otras cosas decía y hablaba de la inviabilidad

igeldo desanexionado pero hete aquí

estas cosas del control político

la comisión jurídica asesora de gipuzkoa emite un informe demoledor demoledor contra esa

de la diputación foral de gipuzkoa tan demoledor que no sigue analizando el contenido del decreto porque dice que no se puede revocar el decreto del dos mil diez que hasta ahí hemos llegado bien

a pesar de innumerables debates habidos en el seno del ayuntamiento de san sebastián en su ayuntamiento pleno a pesar de una mayoría evidente y objetiva que políticamente representa a los ciudadanos de san sebastián y que se opone

además de estos informes de la comisión jurídica asesora y de otros tantos expertos en materia jurídica y económica el diputado general de gipuzkoa militante de bildu

nada de esto no le importa ni la democracia

ni le importa la ley expresada no solo en las normas forales y en legislación competente sino también en informes de la comisión jurídica asesora

a estos que son tan demócratas y decreta unilateralmente

la segregación del oprimido pueblo de igeldo pero afortunadamente afortunadamente vivimos en un estado democrático y de derecho como ustedes saben

unidos al partido socialista y al partido popular aprueban

una moción en la que piden la intervención de los servicios jurídicos y en cualquier caso la interposición de un recurso ante el tribunal superior de justicia del país vasco y como vivimos en un estado democrático y de derecho el tribunal superior de justicia del país vasco como es lógico

de todo este recorrido absolutamente estrambótico llevado a cabo

de perfil ya sea bildu diputación de gipuzkoa con toda claridad

señorías ante lo que nos encontramos es ante la historia de una imposición efectivamente de una imposición unilateral de una imposición

y absolutamente irresponsable que ha carecido de rigor jurídico porque cuando uno gobierna cuando uno pasa de la pancarta a la institución

también tienen la responsabilidad de actuar conforme al rigor jurídico y legal que es lo que no han hecho o hacen solo cuando les interesa y en este caso concreto de la diputación foral de gipuzkoa ni les ha interesado ni desde luego no han hecho no ha habido

democrático a ustedes la democracia una vez más les ha importado bien poco porque no han hecho caso ni a la democracia expresada en juntas generales de gipuzkoa ni a la democracia expresada en el ayuntamiento de san sebastián han hecho unilateralmente lo que les ha dado la gana

no está mal como aviso a navegantes no está mal de lo que son capaces de hacer estos señores cuando tienen la más mínima cuota de poder

que nosotros nos sorprende poderosamente es que ustedes todavía
no se han dado cuenta de que sus compañeros de viaje sémper jauna amaitzen joan mesedez acabo ya señora presidenta

de que a ustedes de que a ustedes no se hayan dado cuenta que con estos compañeros de viaje este es

siempre inevitablemente que yo entiendo que ustedes hayan tenido un interés electoral para permitir que gobiernen en gipuzkoa para permitir que gobiernen en san sebastián para permitir que gobiernen en lasarte

pero cuando ese cálculo electoral perjudica a los guipuzcoanos perjudica a los donostiarras perjudica a los lasartearras perjudica a los ciudadanos

hoy aquí reafirmo con toda contundencia los responsables son los señores de bildu pero ustedes son corresponsables de esto y de otras muchas

sí gracias presidenta buenas tardes bien han sido múltiples las iniciativas que los socialistas vascos sobre el asunto que hoy nos ocupa hemos presentado tanto en el ayuntamiento de san sebastián como en las juntas generales de gipuzkoa porque

en el último año que es cuando la diputación foral de gipuzkoa da traslado al ayuntamiento del escrito de la comisión promotora itsas aurre a fin de que el ayuntamiento se pronuncie sobre la petición que esta comisión formula

el decreto foral seis barra dos mil diez del dieciséis de marzo y que se declare y proclame igeldo como municipio

en la ley reguladora de bases de régimen local las competencias relativas a los acuerdos sobre la delimitación y alteración del término municipal y el ejercicio de acciones judiciales y administrativas son competencias que residen en el pleno municipal

reguladora de las demarcaciones municipales de gipuzkoa establece que corresponde al pleno y a ningún otro órgano municipal

de segregación del municipio este es un proceso de segregación que no es en absoluto un asunto menor señor isasi resulta imprescindible

a la legalidad y a los procesos previstos por el ordenamiento jurídico en aras de garantizar la equidad y la satisfacción de todos los intereses en juego y san sebastián tiene experiencia de desanexión no traumáticas no se trata de imponer

barrios o pueblos que le rodean ejemplo astigarraga procedimiento absolutamente normalizado cumpliendo estrictamente el ordenamiento jurídico y la legalidad y vigente y hoy astigarraga es uno de los ochenta y ocho de gipuzkoa por eso le decía señor isasi que solo desde ese respeto podrá tener la ciudadanía donostiarra y en particularlos vecinos de igeldo la posibilidad de que sus expectativas e intereses sean adecuadamente analizados y abordados

desde premisas estrictamente democráticas y respetuosas con los derechos de todos

ese debate no se podía hurtar a la ciudadanía donostiarra como se ha pretendido por parte de bildu en el ayuntamiento de san sebastián vetando plenos monográficos no dejando hablar al secretario municipal en los plenos en los que se trataba este asunto y por lo tanto

situaciones de incertidumbre jurídica que traicionan abiertamente el espíritu y el objetivo de las normas de convivencia de las que nos hemos dotado la ciudadanía

dieciséis de marzo en virtud del cual se desestimaba la pretensión de segregación del nuevo municipio de igeldo esa desestimación se realizó en su momento en base a una decisión plenaria de san sebastián y no en la época del franquismo fundamentada en que la segregación solicitada no concurrían en ella

que garantizaran una mejor gestión económica o un mejor servicio administrativo a los ciudadanos de igeldo ni contaba igeldo con los dos mil quinientos vecinos indispensables para crear un municipio

en el año dos mil tres al considerar que debía existir una mínima masa crítica que justificara la creación de un nuevo aparataje político administrativo

vecinos y vecinas y no les cuento que podría pasar

a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del gobierno de rajoy que minimiza la autonomía municipal a la mínima expresión pero ese es otro debate lo más insólito señor isasi

de la diputación foral de gipuzkoa y del alcalde de san sebastián ha sido la pretensión de este último de intentar mediante el veto de la celebración de plenos monográficos o no dejando hablar como decía antes al secretario municipal que el pleno de la ciudad no se pronunciara sobre una segregación que afecta al dieciséis por ciento de su territorio

de sus ciudadanos y ciudadanas envolviendo todo esto en un engaño a los portavoces municipales de la oposición en un juego tramposo

de lo que es la interposición de las actuaciones procesales pertinentes para la defensa de los intereses municipales eso ha ocurrido señor isasi en el ayuntamiento de san sebastián

no hace ni un año el grupo socialista presentó ante el asunto de igeldo una enmienda en la que instabamos al parlamento vasco a rechazar la desanexión de este barrio decretada por la diputación foral de gipuzkoa y proponíamos también

al dictamen de la comisión jurídica asesora del territorio histórico de gipuzkoa de trece de diciembre que concluía ese dictamen de la comisión jurídica asesora el órgano consultivo superior de la diputación foral de gipuzkoa concluía que era absolutamente desestimable la segregación de igeldo y que por lo tanto no se podía revocar

el anterior decreto foral y eso se lo han saltado a la torera la diputación foral de gipuzkoa el diputado general y su gobierno es verdad que el dictamen de la comisión jurídica asesora es preceptivo y no es vinculante pero si el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la diputación

que no puede desanexionar igeldo y él hace oídos sordos

desde el punto de vista jurídico se coloca él y coloca a la diputación como institución en una

como conocía los informes técnicos económicos y jurídicos del ayuntamiento de san sebastián

del secretario municipal del director financiero y del jefe de la asesoría jurídica y además conociendo esos informes se mantiene en su posición inmovilista erre que erre yo sigo con mi decreto pase lo que pase pues bueno las actitudes políticas del diputado general y del propio bildu en política además de inaceptables son absolutamente reprobables y reprochables

el proceso de desanexión de igeldo ha sido llevado a cabo por bildu en gipuzkoa de forma unilateral

interés político y partidista y para ello a vulnerado los principios de actuación más elementales de cualquier gobierno democrático que deben ser velar por el interés general por el cumplimiento leal del ordenamiento jurídico y por respetar las decisiones democráticamente adoptadas en las instituciones

y bildu juega con gipuzkoa y con su capital a ser un laboratorio experimental del conflicto permanente estamos en la guerra de las basuras ahora estamos en la guerra de ser como escocia estamos en la guerra de los peajes y ocurrencia tras ocurrencia de bildu en lugar de estar en las instituciones a lo que hay que estar

pues están ustedes mostrándonos día a día y desde bildu la escalada loca

más que evidente hay algo que bildu ha perdido desde el año dos mil once desde junio del año dos mil once es que

ya de bildu nos esperamos en gipuzkoa cualquier cosa señor isasi cualquier cosa y ha logrado que el resto de partidos seamos inasequibles al desaliento

bildu y sus actitudes de verdad lleven al final a pensar entre todos que la razón

hay que centrar la atención en buscar la mejor fórmula de relación

de los dieciséis barrios restantes de san sebastián espero de verdad

ereñotzu se convierte en la primera entidad local menor de gipuzkoa kronika laburra bezain interesantea orduan aldundiko

o igeldo en san sebastián aunque en este caso el ayuntamiento que es el que tiene que cursar la solicitud se opone

aunque no satisface plenamente nuestras aspiraciones hemos recibido con agrado la propuesta

algún portavoz pretendía quitarle importancia a este asunto y no es un asunto menor en absoluto no es ni siquiera digamos un asunto municipal va mucho más allá que todo eso estamos hablando en definitiva de gobiernos en concreto el gobierno de san sebastián y el gobierno que deciden saltarse las leyes y de un modo antidemocrático tomar decisiones contra los ciudadanos por eso es importante y era importante que este parlamento se posicionara en contra de esa actitud permanente de bildu de no respetar la ley la normativa vigente y hacer las cosas que habitualmente ha hecho a lo largo de su historia que es

de una manera perfectamente antidemocrática por lo tanto bildu ha actuado de la manera en que ha actuado siempre de manera antidemocrática porque no entiende los más básicos principios de la democracia y por eso nosotros pretendíamos que este parlamento los grupos democráticos para decir a bildu para decir al gobierno municipal para decir al gobierno de gipuzkoa que esto no puede ser en absoluto en nuestra opinión esta es seguramente la mayor de las corrupciones el incumplir permanentemente la ley

actuar de este modo y tomar decisiones contra los ciudadanos esta es seguramente la mayor de las corrupciones me preguntaba sémper en fin si entendía o no la postura del partido nacionalista vasco entiendo perfectamente la postura del partido nacionalista vasco la entiendo perfectamente y la postura del partido nacionalista vasco no está basada únicamente en razones electorales que también sino que va mucho más allá igeldo

por parte de bildu del derecho a decidir en igeldo evidencia todas las contradicciones y todas las mentiras del nacionalismo vasco

podremos preguntarle y en igeldo qué y en igeldo por qué no y qué es lo que ha dicho el partido nacionalista vasco respecto a la posibilidad de que se independizara

que no se han respetado los procedimientos establecidos y la normativa vigente justo lo que les décimos nosotros permanentemente en relación al derecho a decidir que pretenden imponer para euskadi por eso es un debate que a ellos les incomoda

porque les contradice y porque se evidencian todas las falacias y todas las mentiras del nacionalismo vasco por eso no ha querido entrar a negociar porque es un asunto que les incomoda y por eso prefiere mantenerse en una posición equidistante pero no es solamente por razones

porque bildu les sitúa el asunto del derecho a decidir y el partido nacionalista vasco

no puede darse no puede darse porque tienen que cumplirse la legalidad vigente y los procedimientos establecidos que es justo lo que nosotros con otros grupos venimos defendiendo

de razones razones jurídicas razones legales quizás sean las más importantes pero hay

se trata de prestar los mejores servicios públicos al conjunto de los ciudadanos esto le da absolutamente igual a bildu pero a nosotros no

y es evidente que municipios pequeños municipios con escasa población no están capacitados para ser lo suficientemente de ahí las normas forales que existen en cada uno de los territorios históricos y que vienen a plantear que municipios con mil habitantes no serían por lo tanto eficientes de hecho hay que ir justo hacia lo contrario no hacia

de municipios de pequeño tamaño sino justo lo contrario justo lo que se ha hecho en otros países de europa hay que ir justo hacia la fusión de municipios fuertes que tengan capacidad de gestionar bien los recursos públicos y que sean capaces de prestar los mejores servicios este también es un argumento importante la multiplicación de entes locales es un disparate y el recurso en fin a la identidad o a la historia para defenderlo una soberana tan habitual en los posicionamientos de bildu en fin para terminar y más allá de que obviamente nosotros respetamos

también décimos que hay que hacer pedagogía política y democrática y tenemos que decir que no solamente hay que cumplir la ley sino que además lo que hay que hacer es prestar

hacia nuevos municipios sino hacia fusión de municipios bildu utiliza a los ciudadanos a mayor gloria de sus desvaríos trasnochados y antiguos han llevado a cabo una cacicada monumental se trata de la política de siempre de bildu una política de corto vuelo ilegal antidemocrática y de imposición y aquí también en este asunto lo están demostrando
toma las decisiones contra los ciudadanos maneiro jauna amaitzen joan contra los ciudadanos donostiarras toma las decisiones

guipuzcoanos contra el sentido común a mayor gloria de sus intereses sectarios y quién sabe si a mayor gloria de sus intereses urbanísticos

cuanto antes pueda salir una iniciativa que seguramente sea más importante y es que los partidos con representación en las juntas generales

pacten para sacar a estos señores de esos gobiernos

que el incumplimiento de la ley amaitzen joan y tomar actuaciones en contra

gracias señora presidenta preguntaba el señor isasi

había aceptado que este debate llegara a la cámara bueno eso es una pregunta que nos hacemos muchos con otras muchas cosas bienvenido

en cualquier caso usted hablaba de claridad mire yo creo que aquí en este tema

porque fundamentalmente tiene dos claves de el por qué es un despropósito lo de igeldo porque aquí no se trata de demostrar quién tiene más respeto o menos

por pretender defender un despropósito no tiene más respeto a la voluntad de los

las cosas se miden con tangibles no con esos intangibles a los que ustedes les gusta apelar continuamente y en este caso fundamentalmente se mide con dos uno

probablemente tenga factores históricos también y dos con respecto a la adecuación de las decisiones a la legalidad y en este caso concreto los dos factores se han quebrado

insisto que se ha puesto de perfil siempre interesadamente de perfil pero que cuando ha tocado

pretendidamente torticera e interesadamente ha dado la espalda a la voluntad mayoritaria expresada por los donostiarras a través de su ayuntamiento en pleno que a día de hoy por encima de ejercicios asamblearios

en su pleno sin contar con san sebastián sin contar con la metrópoli opresora el diputado general de gipuzkoa

emulando a ese pequeño dictador al que usted hacía referencia del que ustedes no están tan lejos ni en las formas ni ideológicamente porque los extremos aunque

una cosa que es la falta de respeto a la legalidad y de respeto a la voluntad popular que es la que demuestra

señor maneiro aquí podíamos estar reflexionando sobre por qué determinadas decisiones

simplemente con escuchar lo que nos dicen no hace falta interpretar lo que quieren porque lo cuentan y lo han contado es verdad que el caso de igeldo es especialmente delicado y especialmente espinoso porque toca una materia muy complicada

encontrar la fórmula por la cual meterse pero la realidad

muy incómodo extraordinariamente incomodo hacer oposición a bildu le resulta mucho más cómodo permitir que gobiernen como

como por ejemplo en san sebastián o como por ejemplo en gipuzkoa y no utilizar las herramientas que el estado de derecho permite

moción de censura de quienes suman mayorías para que no gobiernen quienes no la tienen porque ellos creen que electoralmente les perjudicaría hacer eso si electoralmente les perjudica hacer eso no lo hacen pero quienes salen perjudicados en esta coacción señor maneiro

y de gipuzkoa salen perjudicados porque el partido nacionalista vasco no quiere jugársela con bildu y ustedes no se cuanto tiempo me queda señora presidenta pero voy terminando han conseguido una cosa

verdaderamente importante en política yo creo que merece ser reconocida

condicionar permanentemente al partido nacionalista vasco que permanentemente estén mirándoles de reojo que permanentemente estén más preocupados en cómo reaccionan ustedes qué les parece a ustedes determinadas decisiones

y eso hay que reconocerlo que lo han conseguido señor isasi la prueba esta en no solo en los debates que en reiteradas ocasiones se producen en este pleno

es verdad gipuzkoa y san sebastián han sido un banco de pruebas porque probablemente en bilbao nunca el partido nacionalista vasco hubiera permitido lo que ha sucedido en san sebastián eso es cierto y están utilizando san sebastián

no ha importado no ha importado el perjuicio de los donostiarras con tal de no enfrentarse a ustedes eso es cierto

eso es cierto y en bilbao en bizkaia nunca lo hubieran permitido ustedes nunca hubieran gobernado en bilbao porque hubiera habido una moción de censura para que ustedes no gobernaran en bilbao

es verdad el partido nacionalista vasco a ustedes en gipuzkoa les tienen miedo miedo electoral

y todos los pasos que el partido nacionalista vasco dé

van a estar encaminados a que ustedes no les hagan daño pero lo que es el problema la derivada de la ecuación señor egibar que no sabe lo que me alegro que esta

el problema que es muy serio es que de ese interés

salimos perjudicados los sufridos guipuzcoanos lo que nadie nos garantiza es que el día de mañana

sí gracias presidenta la decisión de la diputación

responde señor isasi a algo que es un término vulgar pero es que

y está realizada con premeditación alevosía y unilateralidad y decía usted que no se explicaba por qué este tema estaba en juicio desde hacía mucho tiempo no cuando resulta que desde bildu no se impone nada claro es que entonces igual estamos equivocando algún término

a hacer lo contrario a lo que ha aprobado o han aprobado dos gobiernos minoritarios

que opinaban lo contrario el plenario de las juntas generales de gipuzkoa y el pleno del ayuntamiento de san sebastián claro no tener en cuenta esas dos opiniones y hacer lo que a uno le venga en gana pues si eso no es imposición qué es

bildu está actuando en gipuzkoa como sí la soberanía popular

suyo y por tanto las reglas de la democracia en gipuzkoa y en san sebastián solo se cumplen si esas reglas conducen al objetivo porque en caso contrario lo que recomienda bildu es pasar de todo despreciar instituciones y leyes legajos por cierto como le llama el diputado foral de gipuzkoa a las normas forales

bien pues pasar de legajos pasar de normas forales y que sean los demás el resto de partidos políticos los que pongan el sentido común y no le quede más remedio que judicializar los temas claro y es que así nos andamos desde el año dos mil once y es que no paramos

y esto es dinero público que gastan los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanos guipuzcoanas y donostiarras cada vez que vamos a tribunales esto

es que no sale gratis tampoco económicamente y es que llevamos ya con la no imposición también de las basuras que va para largo claro esto de las no imposiciones

pues en fin suena de verdad que si no es porque el tema

su enjundia y tiene su problemática parecería que estamos en un circo que qué bien no lo estamos pasando todos

más que serio porque están vulnerando las reglas democráticas porque les importa un pepino la leyes

en determinadas generaciones de que aquí lo que importa es lo que yo decido

que tiene que controlar la acción de gobierno opine todo lo contrario da igual ese es el respeto que está buscando bildu para las nuevas generaciones

y eso es grave eso es muy grave yo les decía

que sí y no se ha tenido en cuenta pero creo que yo lo dejo aquí

hay una estrategia por parte de bildu de disolución de lo que es la capital de gipuzkoa es una estrategia sí sí ríanse pero échele un vistazo la izquierda

pretende que colectivos cercanos a su ideología

hacen una demanda también de desanexión es que la alcaldesa de pasaia

alza intxaurrondo bidebieta el alto de miracruz

solo más del treinta por ciento de san sebastián en esa estrategia vamos disolviendo

en qué se queda a ver si hay suerte y eso que llaman ustedes la metrópoli opresora desaparece de una vez como decía un compañero mío a ver si la unen con otxarkoaga y queda un poco ahí diluida también

esa estrategia también es importante y también hay que tenerla en cuenta porque

de qué tienen que ser los municipios y solo aquellos que reúnan y unan la misma ideología son los que hay que fomentar y sí para ello hay que disolver

que va a tener sus consecuencias y creo que debiéramos de ser al menos más responsables con las competencias que nos han otorgado la ciudadanía y sobre todo y fundamental hacer una cultura de que las instituciones sirven

y que el gobierno foral o el gobierno municipal haga lo contrario

de todos los que estamos aquí muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

ejemplo de falacia autodeterminista

de despropósito nacionalista

ni existía lasarte oria y decidió existir y se desgajó desanexionó de hernani de andoain de urnieta y de usurbil y tanto es esto

como geopolítica o alta geopolítica porque hasta cabría recordar que usurbil se opuso por los terrenos de michelín a la creación de lasarte oria casi tanto como rusia está defendiendo

y sebastopol y ahora vamos a hablar en serio

a decidir no es esa frivolidad de la que nos ha hablado el señor maneiro o no sé si algún otro portavoz o que nos causa incomodidad en absoluto ninguna incomodidad

derecho a decidir derecho a decidir tiene un sujeto político y es un pueblo no un pueblo como lasarte oria no un pueblo como barakaldo no un pueblo como zumaia no un pueblo como donostia

o si se quiere una nación ese es el sujeto político del derecho a decidir por mucho que estos de bildu hayan perdido un poco la pinza con el tema de igeldo y nos hayan vendido propaganda pagada con el dinero público de todos los guipuzcoanos y en este tema lamentablemente

nunca hubiera creído que fuera a hacer y es así eskerrik asko eskerrik asko zuri arrizabalaga andrea aber

eh que pasa que sale al reves tu has votado que sí y tu que no berris beste

a ver marcando al revés oye pues a mano alzada hacemos eh no no beste proba bat egingo dugu vamos a hacer otra prueba

sale bien sale bien no osea que esta bien la esta

pero a otras veces ya bueno beti bueno a ver

vale gracias señora presidenta voy a resumir lo más posible porque en fin sí

que el asunto que tenemos sí tiene importancia porque afecta a personas que han invertido unos

de una forma obligada y ahora los tienen atrapados en un concurso de acreedores el caso que discutimos hoy es distinto al que suele ocurrir o está ocurriendo en los últimos tiempos con otras inversiones financieras de bancario aunque esté relacionado con soporte empresarial en el caso que nos ocupa de un colectivo

estamos hablando de las cuotas sociales que de manera obligada tienen que aportar los cooperativitas cuando primero ingresan en la cooperativa y luego

van acumulando y solo pueden rescatar en la jubilación

según los resultados de la empresa cada año y en algunos casos

me parece relevante que es una aportación obligada en general y que solo pueden rescatar al llegar a la jubilación pueden es verdad añadir aportaciones voluntarias que se suman a ese capital pero en cualquier caso es capital social de la vida laboral las dos asociaciones que se han acercado a los grupos políticos que hoy han estado por la mañana ante la sede

para reclamar una interlocución que busque una solución a su problema son por un lado eskuratu que agrupa a los afectados de edesa

a los afectados del resto de fagor electrodomésticos

es un capital que no solo sentido común al ser capital social dice que no es como una aportación financiera ordinaria

lo ha calificado como deuda ordinaria es decir que van a cobrar en un estado de preferencia intermedio van a cobrar detrás de hacienda de la seguridad social de los salarios pendientes pero antes que aquellos

obligaciones subordinadas cobrarán si hay dinero una vez terminada la liquidación de que cobren los primeros que tienen preferencia puedan llegar a cobrar en cualquier caso hay dos tipos de afectados aquí unos que estaban en su vida laboral con el capital social dentro y el concurso de acreedores les ha atrapado esa bolsa de ahorro obligada que tenían en la cooperativa y por otro lado aquellos jubilados que

de poder seguir con la fórmula de prestamo mercantil a la cooperativa con esa fórmula estaban siguiendo en un periodo de aportación como prestamo de ese capital a la cooperativa que es una forma de financiarse estos dos tipos

de personas han quedado atrapados hasta aquí podíamos decir

merecen nuestra atención pero hay un concurso de acreedores que es quien resolverá de alguna forma este asunto pero hay algún otro elemento que yo creo que exige que el parlamento inste

y a las diputaciones a intervenir de forma que ayuden a mil doscientos a implicarse y a dar alguna solución razonable a este asunto y lo digo porque

nos movemos en un marco de solidaridad dentro del mundo cooperativo y por otro lado y muy importante porque

finales del dos mil doce en diciembre concretamente se aplazó el pago de algunos intereses de las aportaciones voluntarias surgieron luces rojas en estos ahorradores pero cuando ya

cuando ya había un plan de viabilidad discutiéndose que se había discutido ya y analizado por el gobierno vasco y por alguna diputación cuando eso estaba ocurriendo algunas personas pidieron el reintegro como pueden hacer legalmente porque estaban jubiladas de esos fondos y recibieron

convenía que los dejaran un tiempo al menos hasta finales de año porque

trabajadores y ese dinero podía ser útil en ese sentido pero en julio de dos mil trece hubo

de fagor electrodomésticos en la cual se planteó

del plan de viabilidad y esa propuesta tenía unos condicionantes que aunque no se votaron eran unos condicionantes que bueno con una perspectiva de seguridad financiera mil doscientos aducía y era por ejemplo entre otros uno concreto

en el plan que se aplazara la devolución de las solicitudes de los prestamos mercantiles de estos ahorros de la vida laboral se aplazara hasta diciembre

de dos mil catorce para facilitar ese tránsito esto era uno de los condicionantes para los cincuenta millónes que pedía fagor a

en esta tesitura se aprueba seguir con ese plan de viabilidad y

y estas personas aceptan no recuperar hasta ese plazo

que antes de que acabe el año entra en quiebra la empresa y quedan atrapados los ahorros de estas personas esto es lo que ha ocurrido

no ha habido aquí mala intención lógicamente ha habido un discurrir de los hechos que iban al hilo de las necesidades de supervivencia de financiación que tenía fagor electrodomésticos tutelado por

estas personas han quedado atrapadas y tienen una relación estrecha en el origen de los fondos con la cooperativa y en la razón por la que han quedado atrapadas con todo el transcurso del debate del plan de viabilidad y de en fin las razones que se hicieron para tratar de sacar adelante

esto así por eso nos parece razonable que en una transacción que yo agradezco a todos los grupos la han firmado todos excepto

a que salga adelante esta iniciativa en la transaccional hablamos por eso de que tanto el gobierno vasco que conoció el plan de viabilidad que lo analizó que lo valoró como las diputaciones

para que las partes en este caso los afectados y

para que no pierdan ese dinero y además no sea una quiebra para la marcha de las empresas eso por un lado además

de lo que es la solidaridad dentro del mundo cooperativo que es un valor muy importante a defender creemos y finalmente se añade que cuando en este parlamento se discuta la ley de cooperativas se arbitre de alguna manera en el articulado

para que este tipo de cosas no es que no puedan ocurrir pero tengan una salvaguarda mayor los ahorros que provienen sobre todo
de la cuota social de los socios de la cooperativa y nada más gracias eskerrik asko

hitza barrio jauna zurea da hitza presidenta sí con su permiso desde el escaño
brevemente para manifestar que mi grupo ha firmado la enmienda de transacción el señor

ilustrativa interesante comparecencia en la comisión de desarrollo económico y competitividad como

nos plantearon la situación preocupante por determinadas denuncias que realizaban de falta de comunicación de los órganos de gestión de la cooperativa del no abono de lo que se les debe de las denuncias de indefensión de información privilegiada etcétera complicada y preocupante somos sensibles desde nuestro grupo en la situación y hemos entendido que la propuesta que realizaba el señor reyes era muy oportuna en consonancia con ello nosotros no planteamos enmienda a la totalidad pero sí una enmienda de adicción que ha sido perfectamente recogida

precisamente a lo que decía finalmente el señor reyes del anunciado proyecto de ley de cooperativas donde se estableciesen en ese nuevo proyecto de ley

la regulación de procedimientos que establezcan controles y garantías sólidas en la participación de los trabajadores en la financiación de las empresas del sector cooperativo bueno en cualquier caso yo creo que es

sí que votaremos a favor de la transaccional estamos de acuerdo eskerrik asko

arratsalde on compartimos toda la explicación que ha dado el señor reyes y creemos también sinceramente que la única solución que se les puede aportar

que han perdido sus contribuciones al final no es otra que la del empleo

hoy el resto de los grupos de esta cámara presentan una enmienda transaccional que recoge en esencia lo que también defendía la enmienda que presentamos desde euskal herria bildu al texto original

interlokuzio iraunkorrak konponbidean lagundu dezake también nos parece interesante que dicha soluciones se plantean en el marco del mundo cooperativo no entenderíamos

ya que no hacemos más que sufrir las consecuencias de un modelo absolutamente injusto e insostenible

son sociedades capitalistas no cooperativas lo cual nos hace por lo menos en nuestra opinión acercarnos a la necesidad de hacer una reflexión sobre un nuevo modelo de relaciones laborales

el control de los medios de producción y las decisiones a tomar en su día a día

sino un modelo en el que los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora azken paragrafoan bada ideia

eta hala proposatu dugu gobernuak kooperatiba lege berria ekartzen duenean como ya avanzamos la semana pasada nos gustaría poder aportar una serie de debates

con el fin de reforzar el modelo cooperativista sus principios y sobre todo dotarlo

que acerque ese modelo a la vertebración social alejándolo de proyectos fracasados ikusi dezakezuenez gure taldearen helburua ez da eztabaida areagotzea gaurko gaiaren

por ello contemplamos vuestra iniciativa de manera positiva pero siempre que sea un primer paso

por el empleo de calidad y bajo parámetros de solidaridad entre los y las trabajadoras un plan de empleo en el que todas las instituciones aporten y estén dispuestas a aportar soluciones en positivo

de un plan de empleo transversal no nos gusta que fagor se pueda vender por áreas de negocio a diferentes empresas privadas que nada tienen que ver con el modelo cooperativista no podemos aceptar que la solución pueda pasar por el empeoramiento de las condiciones laborales y por la precarización de los y las trabajadoras

y laborales y para hacer de esas áreas geográficas anteriormente industriales zonas sin empleo y sin futuro

para tener un futuro las últimas noticias sobre edesa nos desalientan el plan de viabilidad presentado paso de ser descrito como viable a no viable por parte de la consejera de industria en el plazo de días eso no es aceptable los y las trabajadoras de edesa han sufrido una permanente indecisión por parte de mil doscientos ellos y ellas pusieron encima de la mesa una solución

de la viabilidad real no ha sido culpa de los y las trabajadoras sino más bien

el empleo es el gran reto de esta legislatura la reindustrialización de este país la solución ahondemos en las soluciones y hagamos un plan estratégico en común que ayude a darnos un futuro

ni en manos de rajoy las soluciones a la emergencia que tenemos como país se encuentran en empoderar a la clase trabajadora dándole poder de decisión y de actuación en lo económico nadie mejor que los y las trabajadoras para ayudarnos a crear empleo démosle por ello voz y no vendamos lo que nos queda a nivel industrial al mejor postor extranjero

no lo he dejado claro en ningún momento estamos hablando del mismo modelo de empoderamiento que plantea adegi errepikatu

adegik defendatzen duen ereduaren alde ya que mientras ellos pretenden empobrecer aún más a la clase trabajadora explotándola y desuniéndola para aumentar sus beneficios

a que las plusvalías del trabajo reviertan en los y las trabajadoras y en nadie más el modelo cooperativista es un modelo que enlaza con la tradición empresarial de este país reforcemos ese modelo

a ámbitos en los que hasta ahora no ha existido para generar una red más global y que permita sustentar otra manera de hacer economía fuera de los intereses financieros o del beneficio entre todos tenemos que poner soluciones las líneas rojas para euskal herria bildu ya se las hemos expuesto aquí por todo ello votaremos nos abstendremos

solo una aclaración por alguna cosa que se ha dicho no estamos hablando solo de personas jubiladas de ciertos prestamos mercantiles ni solo de las aportaciones voluntarias hay personas atrapadas en este sistema

su cuota social su aportación al capital social ha quedado

es el empleo no sé si los jubilados le van a agradecer que los ponga a trabajar a todos para solucionar la recuperación de su cuota social

decir que hoy evidentemente parece que tenemos un problema de luces

la solución no es que simplemente sea solamente el empleo evidentemente pero así

con el mantenimiento de ese empleo es con el que se garantiza no solo

siga funcionando sino que también se garantiza que los que ya han sido jubilados puedan mantener esas aportaciones y puedan seguir cobrando eso es así besterik ez